gracias presidenta es verdad que esta proposición que ha sido

ha perdido una parte del mordiente dado que no están sentados en el escaño los representantes de eh bildu que no quisieron firmar la enmienda de transacción

en cualquier caso con esta proposición el grupo socialista pretende que el parlamento vasco

expresen el reconocimiento que se le debe a la actividad desarrollada por eudel

un reconocimiento que entendemos se merece esta asociación con una existencia dilatada

y creemos que con una importante hoja de servicio al país en defensa de la autonomía municipal y del bienestar de los ciudadanos

muchos años ha sido en los municipios de euskadi donde se ha jugado buena parte

frente al terrorismo totalitario que eta quería imponer y conviene no olvidar que en esta lucha y esta movilización la asociación de los municipios vascos eudel ha sido

de la democracia y los derechos ciudadanos como lo ha sido igualmente en su función específica una función tan importante como es la defensa de los intereses locales que es un objetivo compartido y con capacidad de unir a los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos y ciudades independientemente del color político que tenga cada alcaldía

es por lo que eudel se ha sabido ganar su condición de interlocutor creíble con el resto de las instituciones vascas y también de interlocutor válido con el gobierno vasco y con las diputaciones cuando se trata de defender los intereses municipales y cuando hay que coordinar y potenciar

el interlocutor indiscutible que deseamos que siga siendo en el futuro como lo ha sido en el pasado como lo fue con el gobierno vasco anterior y buena prueba de ello es que gracias a las propuestas y aportaciones de eudel gracias a los acuerdos que el ejecutivo socialista consiguió alcanzar con la asociación de municipios vascos

y remitir al parlamento vasco un proyecto de ley municipal inédito hasta entonces en la democracia vasca un proyecto de ley

como es ampliamente conocido aunque por suerte y gracias también a nuestra insistencia hay expectativas para que este país cuente con una nueva ley municipal esperemos que en un periodo de tiempo lo más razonable posible una ley un proyecto de ley que el gobierno vasco deberá aprobar y remitir a la cámara en el plazo de un año algo menos ya de acuerdo con la propuesta aprobada el diecinueve de abril pasado en este parlamento

pero creemos que también a las diputaciones forales a intensificar el diálogo y a buscar con eudel los acuerdos precisos por eso precisamente es por lo que es más necesaria que nunca hoy prestigiar legitimar

y pensamos que tiene que seguir haciendo la asociación de municipios vascos sobre todo cuando vemos que hay maniobras muy claras tendentes a cuestionar la legitimidad de eudel

descalificaciones continuas y acusaciones infundadas de falta de democracia interna descalificaciones y acusaciones que se manifiestan y no por casualidad en aquellos municipios donde bildu gobierna y trata de imponer un modelo de asociacionismo municipal que no es el que ha venido rigiendo hasta la fecha

por eso con esta proposición queremos reafirmar y garantizar la pervivencia de un modelo democrático y plural que es el que ha regido hasta la fecha el asociacionismo municipal vasco un modelo abierto concebido para la defensa de los intereses específicos de los ayuntamientos y no al servicio de dogmas ideológicos que le son ajenos un modelo que es garantía de solidez y de eficacia

no intereses de parte superando limitaciones partidistas porque a todos los alcaldes y alcaldesas a todos los ayuntamientos sean del color político que sean lo que les interesa es que los ayuntamientos cuenten con recursos y con competencias para desarrollar políticas de bienestar

y les interesa contar con un marco legal que garantice desde la seguridad jurídica su trabajo y evite que tengan que mendigar de otras instituciones como muchos de ellos

queremos hacer una eudel que reivindique el papel de los ayuntamientos en la puesta en marcha de las mejores políticas de bienestar para los ciudadanos

y de la independencia como pretende euskal herria bildu con la reconstrucción de udalbiltza

no están para estas cosas queremos una asociación que sea de verdad la voz de los ayuntamientos y no la correa de transmisión de quienes tratan de manipular

que desde luego no es la nuestra ni es la que hemos conocido hasta el presente queremos en definitiva mantener eudel como un espacio de entendimiento entre diferentes al servicio de reivindicaciones comunes y compartidas donde nadie pueda imponer vetos ideológicos que otros tratan de establecer allí donde gobiernan

que trata en primer lugar como he dicho al principio de expresar un reconocimiento expreso a la asociación de municipios vascos

y como interlocutor válido y eficaz con el resto de instituciones para la coordinación y el consenso de políticas públicas y también lógicamente

insta en segundo lugar al gobierno vasco y a las diputaciones forales a seguir trabajando con eudel

en reconocimiento de su carácter de interlocutor preferente y en tercer lugar hace también un llamamiento a todos los municipios del país vasco a participar de manera activa en eudel y en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus estatutos y termino

alcanzar y que representa dos tercios de esta cámara y creo que es un tema importante que le da un apoyo

buenos días como se ha recordado eudel se funda en el año mil novecientos ochenta y dos y el objetivo

para lo que luego tendré que compartir con ustedes es doble

los intereses locales ante otras instituciones como ya también se ha dicho los estatutos de eudel recogen expresamente el fomento y defensa de la autonomía municipal la defensa y representación de los intereses generales de los asociados

la coordinación y dinamización para la cohesión de los ayuntamientos vascos fomentando el intercambio

y difusión de buenas prácticas y el desarrollo del espíritu europeo de los entes locales entre sus objetivos fundacionales entre los fines que recoge

esos y solo esos son los fines declarados por eudel

que mueven su constitución trabaja por lo tanto para poner en común políticas municipales como por ejemplo y los que hemos tenido trayectoria municipal lo sabemos establecer

para que sean comunes a todas las instituciones o establecer criterios generales a los que todos los ayuntamientos vascos puedan acogerse con carácter no con carácter obligatorio

pero sí con carácter coordinador y uniformizador

y dejando la historia a un lado y dejando lo que ha supuesto eudel de momento a un lado cuál es el problema cuál es el motivo por el cual hemos llegado a un punto en el que se hace necesaria o se hace oportuna o resulta oportuna mejor dicho una proposición no de ley como la que nos plantea hoy el partido socialista a nuestro juicio hay dos motivos fundamentales que han ido debilitando eudel

algunos de carácter técnico en la utilización equivocada técnicamente de eudel y otros de carácter político

que han ido debilitando la unidad de criterio dentro de eudel como por ejemplo fue en el año dos mil ocho la negociación entorno a lo que se denominó udalhitz

serias discrepancias internas dentro de eudel fundamentalmente entre dos partidos políticos mayoritarios en eudel como son el partido nacionalista vasco y el partido socialista esa decisión la decisión derivada de la negociación de udalhitz quebró

la unidad política que hasta entonces había existido en eudel o ese criterio general que había sido compartido

y años sucesivos el ipc más el uno por ciento hubo una cesión ante determinado sindicato por parte de quien ostentaba la mayoría en eudel y resquebrajó como les decía la unidad de criterio que hasta entonces había

y por otro lado un hito político que debilitó de una manera grave e importante eudel fue el acuerdo para la constitución para la ruptura de eudel tras el pacto de estella

de udalbiltza udalbiltza que nació exactamente para lo contrario de lo que significa eudel y que he numerado que he

para constituir una especie de democracia orgánica en virtud de lo cual

sirvieran no a los intereses de los ayuntamientos vascos y de los ciudadanos sino que sirvieran para la consecución determinada soberanía esos dos aspectos a lo largo de estos treinta años han supuesto

a eudel dañar la credibilidad de eudel y desde luego dañar también la fuerza política

eudel tenía entre los municipios de euskadi hoy afrontamos y digo afrontamos porque eudel es de todos

un nuevo reto afronta el reto de los que hoy no están que consiste en cargarse eudel para rehabilitar

a rehabilitar esa pretendida representación orgánica que ayude a la consecución de otra serie de objetivos que poco tienen que ver con el municipalismo al grito de es demasiado técnico o eudel adopta decisiones demasiado técnicas necesitamos constituir

para conseguir nuestras aspiraciones soberanistas y por lo tanto los intereses municipales los intereses de coordinación los intereses de asistencia técnica los intereses de intentar homogeneizar determinada normativa municipal

quedan relegados una vez más a un bien superior

por eso nosotros creemos que es tan importante que hoy exista un acuerdo como el que hemos firmado entre el partido socialista el partido nacionalista vasco y el partido popular es un acuerdo

que transmite un mensaje inequívoco

a nuestros propios partidos representados en esos ayuntamientos y a los ciudadanos pero también a nuestro juicio estamos hoy lanzando un mensaje importantísimo a los que hoy no están

los que hoy sí estamos aquí compartimos una cosa por encima de otras consideraciones compartimos una cosa por encima de otras aspiraciones y es que los ayuntamientos están para representar al ciudadano y para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos

que se dediquen en exclusiva a defender los intereses cotidianos de los ciudadanos y a coordinar las políticas que hay que desarrollar en los ayuntamientos que son políticas municipales pensando exclusivamente en los intereses de los ayuntamientos y de los ciudadanos y por eso hay que felicitarse desde luego señor pastor pero

despistarnos tampoco yo creo que la experiencia vivida los errores cometidos a la hora de utilizar una herramienta válida y útil como es eudel

determinadas herramientas que deben de estar al margen de luchas partidistas

pero que no pueden afectar a órganos que al final prestigian porque le dan valor y porque lo hacen más útil en este caso que prestigian eudel

hemos accedido a firmar y hemos llegado a un acuerdo para
la aprobación y sacar adelante esta enmienda transaccional muchas gracias eskerrik asko semper jauna

se reconoce el carácter de interlocutor preferente además de referente del municipalismo vasco que ostenta eudel y recordar que la legislación sectorial

reconoce a eudel directamente como la asociación de municipios de mayor implantación así se reconoce en numerosas leyes en decretos en reglamentos y en un

entendemos oportuno solicitar el reconocimiento institucional de eudel es por ello que instamos al gobierno vasco a que en el proyecto de ley municipal

reconociéndole de manera expresa su representación como asociación de municipios y entidades locales con mayor implantación en el ámbito territorial de la comunidad autónoma

la pluralidad y la capacidad de llegar a acuerdos las comisiones de trabajo y mesas de negociación de eudel han sido frecuentemente artífices

gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señor

nosotros estamos básicamente de acuerdo con casi todo lo que aquí se ha planteado por los diferentes portavoces y efectivamente estamos de acuerdo

lo fundamental de lo que se debate y con lo fundamental de lo que ustedes han llegado a transaccionar y han planteado en esa enmienda de transacción nosotros estamos de acuerdo con los cuatro primeros puntos de la enmienda de transacción y no estamos de acuerdo con el punto cinco alguno de los portavoces ni siquiera se ha referido

debo decir efectivamente que estamos totalmente de acuerdo

al apoyo que eudel merece y el reconocimiento que eudel merece y que debemos

trabajando en defensa de los municipios y en defensa de los intereses de los ciudadanos por lo tanto

de dudas y nos parece perfectamente bien que este parlamento manifieste su apoyo expreso su expreso reconocimiento a la asociación de municipios eudel

de que este parlamento inste al gobierno vasco y a las diputaciones forales a seguir trabajando y colaborando con eudel

de manera activa en eudel y nos parece perfecto que

una ley municipal y que en ese proyecto de ley municipal que vaya a remitirse a esta cámara

de eudel con esto por lo tanto estamos de acuerdo y nosotros votaríamos a favor de esos cuatro primeros puntos no estamos de acuerdo con el quinto punto

que sean necesarias para que cualquier modificación de la legislación básica en materia municipal

del entramado institucional vasco nosotros a esto nos opondríamos creo que un parlamento no está para o no debería estar para pedir a un gobierno o a otro que ante cualquier tipo de modificación legal

la singularidad en este caso foral del entramado institucional vasco yo creo que los parlamentos están para instar a los diferentes gobiernos a impulsar todos aquellos cambios que sean necesarios más que a defender determinadas singularidades que en este caso además no nos interesan

a este gobierno y al gobierno de españa a impulsar las reformas que los ciudadanos necesitan más que cualquier otra cuestión y es obvio que a día de hoy españa

una reforma en profundidad de la administración y que necesita evidentemente reformar el estado autonómico para

federal simétrico que no tiene nada que ver por cierto con el estado federal asimétrico que algunos plantean o con el estado confederal que otros plantean

todas las modificaciones legales que sean necesarias incluida la modificación de la constitución española para alcanzar un estado federal simétrico cooperativo

el gobierno central tendría una serie de competencias indelegables entre las cuales se encontrarían las sanidad y la educación recogidas expresamente en la constitución española

de las diferentes comunidades autónomas esto es lo que los ciudadanos vascos y el conjunto de los ciudadanos españoles necesitamos

a que defienda la singularidad foral sino que lo que necesitamos es que se impulsen los cambios legales necesarios para

que se supriman las diputaciones provinciales y que se supriman las diputaciones forales e insisto una reforma de la administración local

algo de lo que ustedes no hablan y que ustedes todos de la mano rechazan de manera contundente que es la necesaria fusión

de la reforma de la administración local hay que volver a poner encima de la mesa que de defender a los municipios además de defender a eudel lo que hay que hacer es impulsar esas reformas que nosotros consideramos que son absolutamente indispensables hay que hacer posible la racionalización y la sostenibilidad de la administración local

incluida la fusión de municipios para poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos las instituciones no son un fin sino un medio

un medio y no puede ser considerado como un fin

que se inste al gobierno a defender determinadas singularidades es el entramado que nosotros tenemos y cómo podemos modificarlo para que los ciudadanos reciban los mejores servicios públicos posibles

quería poner encima de la mesa y sobre el que queríamos insistir la necesaria de municipios algo que se ha dado en todos los países de nuestro entorno en todos los países de europa se ha dado en las últimas décadas un proceso de fusión municipal ustedes no quieren dar ese paso porque ustedes quieren defender

sus propias posiciones de partido político pero a los ciudadanos sí que les interesaría

lo que les interesaría es impulsar todas estas reformas que son necesarias para defender de la mejor manera posible a los ciudadanos y para poder darles

posible en fin no voy a explicar nuevamente las características del mapa municipal vasco tenemos doscientos cincuenta y uno municipios la mayoría

esto en nuestra opinión no tiene ningún sentido lo cierto es que muchos ayuntamientos por su escasísima población y sus cada vez más menguados recursos arrastran una existencia fantasmal y son incapaces de proyectar siquiera una mínima sombra de prestación de servicios públicos esto es lo que habría que cambiar

anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses de los partidos políticos que efectivamente pretenden que nada cambie para

no puedan ser perjudicados por lo tanto nosotros estaríamos de acuerdo efectivamente con los cuatro primeros puntos defendemos a eudel reconocemos el trabajo de eudel debe seguir adelante defendemos el municipalismo defendemos a los ayuntamientos pero no puede evitar que planteemos determinadas modificaciones porque el objetivo fundamental es defender los intereses de los ciudadanos sabemos que existen

sino de mentalidad es complicado convencerles a ustedes de esta necesidad ya sabemos que la sociedad española es una sociedad muy tradicional que en los últimos tiempos les cuesta y sobre todo a sus representantes políticos

algunas cuestiones pero nosotros seguimos poniéndolo encima de la mesa ya digo existen dificultades que no son técnicas sino de mentalidad el sentimiento de identidad o el arraigo al terruño a la patria chica al pueblo otras quizás son más técnicas

una determinada fusión cómo se hace cuáles son los pasos cómo se acuerda cómo se consensúa en todo caso nosotros debemos decir que propuesta de fusión de municipios lógicamente el pueblo no desaparecería en ningún caso y en todo caso y ese es el objetivo los ciudadanos sí que podrían recibir

cosa que a día de hoy no ocurre por tanto españa necesita reformular y refondar el modelo autonómico para hacerlo viable necesita un estado federal simétrico necesitamos suprimir las diputaciones provinciales y forales necesitamos fusionar ayuntamientos

de competencias algunas competencias deberían ser trasladadas a europa otras deberían ser trasladadas a las comunidades autónomas y otras deberían ser trasladadas a los ayuntamientos y obviamente necesitamos una en euskadi una ley municipal una necesidad evidente e indudable para

una ley que garantizase a los ayuntamientos autosuficiencia financiera en plena contradicción con las tan habituales políticas clientelares y con la dependencia financiera

es en nuestra opinión lo que debería hacerse insisto está muy bien decir que eudel ha hecho un buen trabajo así ha sido hay que reconocerlo pero esto

determinadas reformas todas estas en nuestra opinión son indispensables y es indispensable la reforma de la administración local y un proceso de fusión de municipios

nos encontramos ante una iniciativa y un tema clásico y habitual de este parlamento el tratamiento dispensado por el estado

al menos en dos o en tres ocasiones pudimos debatir

asunto nosotros pensamos que es un tema importante en definitiva se trata de una iniciativa que lo que trata de defender es la laicidad del estado la separación entre estado y las diferentes iglesias por lo tanto nosotros pensamos que

es algo que está muy relacionado con la propia democracia y esto es lo que hay que defender otro de esos cambios que españa necesita y que durante tantos años

por los diferentes gobiernos de todos los colores podemos recordar que efectivamente ya aproximadamente hace dos o tres años planteamos esta iniciativa se planteaba esta iniciativa por parte de algún otro grupo

al gobierno de españa en aquel momento gobierno socialista a dar todos estos pasos que volvemos a plantear en esa enmienda de transacción sabiendo las dificultades

a dar los pasos que nosotros consideramos necesarios ahora parece que es todavía más complicado porque efectivamente el gobierno de españa está en manos del partido popular

absoluta en todo caso queremos plantear nuevamente esta propuesta aunque sea de manera testimonial porque nos parece que es lo cierto es que no hay demasiadas cosas que explicar más allá de leer la enmienda de transacción que nosotros hemos conseguido firmar con el grupo socialista a quien agradecemos creo que es perfectamente clara y que en esa enmienda de transacción

proponemos proponemos instar al gobierno de españa a analizar el marco de relaciones creadas con la iglesia católica y con otras confesiones religiosas definidos por los acuerdos con la santa sede y los acuerdos de cooperación de mil novecientos noventa y dos y la revisión de los mismos con el fin de asegurar y defender la laicidad del estado como un elemento consustancial a la idea de libertad

que con la idea de democracia creo que esto es lo fundamental asegurar y defender la laicidad del estado como un elemento consustancial a la idea de libertad e igualdad proponemos instar

la oportuna reforma del acuerdo de tres de enero de mil novecientos setenta y nueve con la santa sede sobre asuntos económicos y la ley orgánica siete barra mil novecientos ochenta de cinco de julio de libertad religiosa

los mecanismos y criterios necesarios y esto es lo importante para distinguir entre las actividades de la iglesia católica y las restantes confesiones religiosas

de aquellas otras funciones o actividades de índole social o asistencial y de los rendimientos de aquellos bienes o actividades afectos a cualesquiera explotación de índole

de que las actividades de índole social o asistencial tengan los mismos beneficios fiscales que los que disfruta cualquier otra entidad sin fin o ánimo de lucro y por otro lado las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe dogmas o cultura religiosa que no tienen que ser sustentadas y apoyadas por el estado

teniendo a efectos impositivos la misma fiscalidad que cualquier otro sujeto pasivo en las mismas condiciones proponemos también que el gobierno de españa lleve a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la iglesia católica y del resto de confesiones religiosas

que quiera llamarse laico y por otro lado modificar la ley de haciendas locales y la ley de mecenazgo y fundaciones para que su regulación se adapte a la nueva situación

para impedir que la iglesia católica se equipare a las administraciones territoriales y corporaciones de derecho público y pueda inmatricular inmuebles y terrenos emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito el acuerdo sobre asuntos económicos entre el estado y la santa sede

referencia que en la actualidad debe entenderse realizada de forma inequívoca al impuesto sobre bienes inmuebles los inmuebles que

serían los siguientes siempre que su titular sea uno de los entes mayores de la iglesia católica los templos y capillas destinados al culto y asimismo sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral la residencia de los obispos de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas

y sus oficinas parroquiales los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas

de disciplinas eclesiásticas y finalmente los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes congregaciones religiosas

consagrada para el resto de entidades de la iglesia católica siempre que se dediquen a actividades religiosas benéfico docentes médicas u hospitalarias o de asistencia social se efectúa una remisión a los beneficios establecidos para las entidades sin fines lucrativos

los distintos acuerdos de cooperación establecen la exención en el ibi de determinados inmuebles pertenecientes a las comunidades que forman parte de la federación de comunidades israelitas a las iglesias integradas

y a sus comunidades miembros tales inmuebles son unos cuantos que aquí no voy a citar porque creo que no merece la pena no quiero tampoco que este debate pueda convertirse en un debate técnico es un debate claramente político es un debate en defensa de la laicidad del estado y de la supresión de todos aquellos privilegios que las

vienen disfrutando desde largos años por lo tanto nuestra propuesta es para suprimir todos esos privilegios

acuerdos y en determinadas leyes que nosotros proponemos modificar y que proponemos cambiar efectivamente esta no es una iniciativa digamos anticlerical ni antirreligiosa sino que es una iniciativa laica una iniciativa que pretende defender el laicismo que pretende defender

entre iglesia y estado no vamos a cuestionar la labor realizada por las diferentes iglesias por las diferentes confesiones religiosas y especialmente por la iglesia

no haya ningún tipo de privilegios y de que se den los pasos necesarios para que el estado español sea realmente un estado laico que es lo que nosotros queremos que sea

muy oportuna y muy necesaria siempre lo es y ahora seguramente más estamos en una época recortes sociales estamos en una época de dificultades presupuestarias estamos en una época en la que las diferentes formaciones políticas plantean incrementos de impuestos que deberían ser pagados lógicamente por el conjunto de los ciudadanos en estas circunstancias parece razonable pedir también a la iglesia católica exigírselo a través de los cambios legislativos que sean necesarios

que ellos también paguen los impuestos que en nuestra opinión les debería corresponder

de bajada de la recaudación de propuestas por parte de los diferentes partidos políticos para incrementar

lo normal es que se propongan medidas pospuestas durante demasiados años propuestas que no tienen otro objetivo que suprimir privilegios garantizar la necesaria laicidad del estado y que todos paguen y aporten a las arcas del estado en fin esta es la propuesta que nosotros defendemos

esa transaccional con el grupo socialista no saldrá adelante no será apoyada y el gobierno de españa

ninguna intención de impulsar todas estas reformas que sean necesarias pero valga al menos como testimonio de que en este parlamento también hay determinados grupos políticos que pensamos que son necesarias impulsar esta serie de cambios iniciativa oportuna y necesaria que lo que pretende es suprimir determinados privilegios de los que goza la iglesia católica

religiosas se trata de que todos paguen y aporten al sostenimiento de las cargas del estado

gracias presidenta consejeros consejeras señorías buenos días la enmienda que hemos transaccionado con upyd pretende por un lado avanzar en la laicidad del estado y en la autofinanciación de la iglesia católica y del resto de confesiones religiosas a través del análisis y reforma de los acuerdos vigentes con las confesiones religiosas modificando también la ley de haciendas locales y la ley de mecenazgo y fundaciones que recogen determinados beneficios fiscales

situarnos en el tema de la financiación de la iglesia católica y de las confesiones religiosas desde un punto de vista objetivo supone reconocer que la iglesia católica cuenta fundamentalmente

por el cual el estado se compromete a colaborar con la iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico con respeto absoluto al principio de libertad religiosa según el acuerdo económico con la santa sede y las leyes vigentes

los demás no en el ámbito municipal se produce la exención del impuesto de construcciones e instalaciones y obras los permisos de obras y las contribuciones especiales

una cuestión bastante residual en el día de hoy ahora bien la realidad cierta objetiva y comprobada por la denuncia de muchos ayuntamientos es que se viene realizando

así como de las leyes que se amparan en los mismos de forma que lo que está ocurriendo en muchos casos es que la iglesia católica y otras confesiones pero fundamentalmente la iglesia católica

tampoco paga el ibi por un importantísimo patrimonio de inmuebles que posee

dándose incluso la circunstancia de que no es un patrimonio ocioso el que se posee sino que por él la iglesia católica percibe rentas importantes

hoy ya son muchos los municipios en españa que están solicitando a través de las múltiples iniciativas que están realizando incluida la de recurrir a los tribunales de justicia

una aplicación rigurosa de la normativa vigente para que la iglesia católica y las demás confesiones religiosas paguen el ibi por aquellos inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto solicitándose también la actualización del padrón de bienes e inmuebles

en los acuerdos de mil novecientos noventa y dos que la federación de entidades religiosas evangélicas la federación de comunidades judías de españa y la comisión islámica tienen con el estado y así por acuerdos convenios o disposiciones legales se financian actividades religiosas educativas culturales y de integración social y las demás confesiones religiosas es decir aquellas que figurando en el registro de entidades religiosas no tiene el acuerdo con el estado carecen de financiación pública

creada por el ministerio de justicia financia proyectos que contribuyen a una mejor integración social y cultural de las minorías religiosas de españa en tanto que estas

las confesiones no católicas con acuerdo de cooperación con el estado o con notorio arraigo como son la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días la iglesia cristiana de los testigos de jehová el budismo y la iglesia ortodoxa es decir

el compromiso económico entre el estado y la iglesia católica se ha gestionado de diversas formas y ha experimentado modificaciones

al modelo actual de asignación tributaria por el que el gobierno entrega a la iglesia

de la declaración de la renta de los contribuyentes que así lo especifican en su declaración y si bien hoy la cuantía de la percepción que recibe la iglesia católica

es variable y depende del número de ciudadanos y ciudadanas que eligen la opción de contribución a la financiación de la iglesia católica y de la propia cuota íntegra de su declaración en el irpf así como de la evolución de ambas variables en el tiempo también es cierto que está absolutamente en entredicho la declaración que la propia iglesia católica hace en el acuerdo económico de la santa sede que firmó con el estado español

en su artículo dos punto cinco respecto a su propósito por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades además de estos sistemas de financiación en españa tenemos la ley de mecenazgo la ley cuarenta y nueve barra dos mil dos a la que se acogen organizaciones sin ánimo de lucro

con el fin de obtener también beneficios fiscales por todo ello

el acuerdo de mil novecientos setenta y nueve los acuerdos de cooperación de mil novecientos noventa y dos la ley de mecenazgo la ley de haciendas locales

y en vista de la coyuntura económica presente debemos lograr que los esfuerzos que todos estamos haciendo ciudadanía administraciones empresas e instituciones

también sean compartidos por las confesiones religiosas y especialmente por la iglesia católica al ser esta la propietaria de la inmensa mayoría de los inmuebles

y en este contexto de crisis y ante la grave situación económica que vivimos con un día sí y día también padeciendo ajustes económicos y recortes sociales y cuando los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano

no parece ni razonable ni coherente que el estado impida y limite la obtención de recursos económicos tan fundamentales para los ayuntamientos

y la recaudación de otros impuestos como el icio que tienen una importancia clave en el peso recaudatorio

que tienen los ayuntamientos por eso los socialistas hemos defendido y defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social

contribuyendo a la cohesión social la regla básica de un sistema fiscal justo

y más aún especialmente en la actual situación de crisis económica

y que cada vez sufren un mayor número de ciudadanos las instituciones públicas deben contar con mayores recursos para poder atender a los que peor lo están pasando

y que mejor conocen la realidad de la ciudadanía son los que están en mejores condiciones de hacer ese trabajo indispensable de atención y asistencia

el real decreto veinte de treinta de diciembre de dos mil once de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público que es un real decreto que insta a las corporaciones locales a una subida del ibi

a incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía e instituciones parece de todo punto de vista lógico y coherente promover la equidad

incluidas las confesiones religiosas y cuando se está tramitando el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local por el gobierno del estado

y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales como principios rectores que deben presidir las actuaciones de la administración pública tanto la iglesia católica

ajenas al esfuerzo que se está pidiendo a la ciudadanía y a las propias administraciones públicas la iglesia católica y el resto de confesiones religiosas manifiestan su voluntad de autofinanciación pero lo cierto es que los hechos no corroboran sus declaraciones de ahí que solicitemos en esa enmienda transaccional el establecimiento de un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la iglesia católica y del resto de confesiones religiosas porque estamos convencidos que pueden y deben darse iniciativas que supongan un avance cierto y que estimulen la eficacia

incluida la de la iglesia católica y por último instamos a la reforma de la ley hipotecaría

inmatricular inmuebles y terrenos emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito

a los obispos actuar como fedatarios públicos y poner a su nombre sin dar cuentas a nadie cualquier edificio cuya propiedad nunca haya estado registrada las diócesis españolas se han hecho así con miles de inmuebles miles de inmuebles

no consiga la mayoría necesaria para salir adelante y ser aprobada pero este debate

cuando está la justicia o al menos el principio de justicia en entredicho muchísimas gracias eskerrik asko corcuera andrea

evidentemente es que pedimos un trato igualitario

decía el señor maneiro que es un tema clásico diría que es un tema eterno se trató

y estamos hoy en mayo de dos mil trece hablando de lo mismo luego yo recomendaría al señor maneiro que para mayo de dos mil catorce apunte en su agenda porque no hay que perder estas bonitas

hablando del mismo tema de las relaciones económicas entre iglesia y el estado

que haya consultado al diccionario para comprobar el sentido y la expresión de la palabra laico o laicismo

la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente la del estado

a la independencia del estado respecto a la religión pero no habla para nada de las subvenciones del estado a las diferentes confesiones religiosas y por qué pues claramente por el hecho de que el estado subvencione las creencias de gran parte de sus conciudadanos

no es el subvencionador sino siempre el subvencionado que es la iglesia

y esto no sabemos si es bueno o malo pero el tiempo se encargará de decirlo si es bueno o si es malo y el estado la administración pública subvenciona en casi todo

no pensará que está pagando el coste del espectáculo no porque existen subvenciones al club y porque los partidos se juegan en un hermoso campo que ha sido pagado por la administración pública

desembolsar la cantidad suficiente para pagarlo luego deducimos que el fútbol está fuertemente subvencionado por la administración pública

y paga los veintinueve euros y medio de la entrada más cara del kursal se dará cuenta de que no está pagando ni siquiera el veinte por ciento del coste real del concierto por qué por que evidentemente la sinfónica de euskadi toca en una infraestructura que es el kursaal pagado por la administración pública y porque también fuertemente subvencionado por gobiernos y diputaciones

por qué vamos a negarnos que el mismo estado subvencione otra actividad que engloba

de la fe religiosa usted confunde el estado laico con el estado totalitario y como me imagina que tampoco habrá acudido al diccionario

que ejerce fuerte intervención en todos los ordenes de la vida estatal y su propuesta de hoy es totalitaria porque usted habla de un calendario para la completa

y del resto de todas las confesiones religiosas y usted sabe que esa autofinanciación es la condena de todas las prácticas de las creencias religiosas en este país porque sin subvención evidentemente no podrían sobrevivir su propuesta es la famosa frase que se lo paguen ellos y esta es una frase de contenido totalitario porque el estado está para subvencionar

la práctica de la fe de cada cual la práctica del deporte o la práctica de la cultura el estado laico no es menos laico por el hecho de subvencionar la práctica religiosa el estado laico sigue siendo independiente a la religión

porque al hablar de subvenciones a diferentes prácticas religiosas estamos hablando de subvenciones

acude alguna vez al mes a las diferentes prácticas religiosas y esa cifra impone respeto porque ya no hablamos ni de fútbol ni de concierto nos estamos refiriendo a la mitad de los ciudadanos de este país llamado euskadi

hacia la práctica religiosa de la mitad de mis conciudadanos porque además esa subvención pública a las diferentes iglesias no es una ayuda directa a las iglesias mismas

de ciudadanos vascos que pueden cumplir con sus actos religiosos

a esa mitad de la población que acude con regularidad como mínimo una vez al mes

el estado se lo da a las iglesias para que estas mantengan el culto

la práctica de la fe del cincuenta por ciento de este país creo que no existe ningún otro asunto subvencionable que aglutine a tal cantidad de población ni la suma del deporte la cultura

de la práctica religiosa y creo que es el grupo más importante en cuanto a cantidad

y dice que las actividades de promoción o proselitismo de la fe deberían crecer de beneficios especiales y tampoco estamos de acuerdo con este punto

no es quién para dividir las cantidades y explicar a las diferentes iglesias

cuando el estado subvenciona el fútbol no le dice al club en cuestión que lo dedique al fútbol base sino que le entrega la cantidad y el

se lo da para que la orquesta en cuestión lo invierta como mejor pueda

por último recordarle que el estado laico democrático tiene la obligación de asegurar el acceso de sus ciudadanos a las prácticas religiosas y este acceso parece que necesita de subvenciones públicas no hay práctica más hermosa que ayudar a quienes no piensan como nosotros y un estado laico

al ayudar y al subvencionar a una mayoría a los ciudadanos en sus prácticas religiosas lo contrario lo que trasciende de su propuesta sería propio de un estado totalitario y pienso que a estas alturas del siglo veintiuno a nadie le gustaría vivir en un estado totalitario nuestra enmienda

insta a las cortes generales a revisar el acuerdo con la santa sede sobre asuntos económicos

una definitiva harmonización y homologación de las relaciones económicas existentes entre el estado y las diferentes confesiones religiosas besterik ez eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor maneiro dice que ha venido a hacer testimonialismo

suprimir privilegios que esto no es una iniciativa antirreligión es testimonialismo

lo mismo que hizo hace dos años usted en este parlamento por supuesto que no es antirreligioso usted respeta

usted solo pide solo pide que se renueve se anule los acuerdos con la iglesia católica

en cierta contradicción con lo que rosa díez decía hace año por estas fechas en el congreso de los diputados diciendo hombre no vamos a hacerle a la iglesia católica peor que a las demás no usted ha venido a eso simplemente y yo

con los grupos políticos alucino con el partido socialista obrero español

digo que alucino porque que nos vengan todos aquí a decir que hay que renovar el acuerdo de la santa sede del año mil novecientos setenta y nueve claro y todos se olvidan que ese acuerdo ya se renovó

sabe cuándo se renovó el veintidós de septiembre del año dos mil seis con un gobierno del partido socialista obrero español encabezado por el señor rodríguez zapatero claro claro por lo tanto por qué nos remiten al acuerdo

en el año dos mil seis en el año dos mil seis si saben que

fundaciones asociaciones de utilidad pública etcétera etcétera

a decir que es que la iglesia católica tiene privilegios y que hay que suprimirlos

ya se ha quedado tranquilo nos parece muy bien ahora le voy a decir una cosa no sé si

y el partido socialista lo tuvo muy claro hace un año en el congreso de los diputados ustedes votaron en contra de esto

sí sí sí ustedes votaron en el congreso de los diputados hace un año

partido socialista y upyd en contra de la propuesta que había sobre la mesa para la reforma de la financiación de la iglesia católica sí sí sí sí y por cierto el primer párrafo de la transacción que se votó allí es calcada a la que nos ha traído usted hoy en su primer párrafo calcado nos dice usted

yo tenemos un tribunal constitucional es que todo esto algunos ya lo han llevado al tribunal constitucional y

que los sistemas que hay con las diferentes iglesias no implica que

es el que da doctrina y lecciones aquí a todo el mundo de lo que es ser laico y lo que

es un tema resuelto hace muchos años por el propio tribunal constitucional no solo respecto a los acuerdos con la iglesia católica también respecto a los acuerdos con las otras iglesias la evangélica la israelita y la islámica como le he dicho dice hay que suprimir privilegios

fiscales en esta materia pues si hay privilegios fiscales será porque el partido socialista obrero español los acordó así en el año dos mil seis y nosotros tenemos que decir que no es cierto que no es cierto no los hay

que la fundación pablo iglesias o que los sindicatos con una diferencia señor maneiro

es decir que prefieren que parte de sus impuestos vaya por ejemplo a caritas porque a lo mejor se sienten mejor atendidos que por ese estado laico que usted plantea y le voy a dar otro dato para su información en los últimos tres años se ha incrementado en uno millón en los que marcan la casilla de la x

y cada vez más por desgracia yo lo único que espero
no tenga que ser uno de los beneficiarios de caritas en los próximos años eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko txandan

sí gracias presidenta en primer lugar debo decir que es la primera vez que upyd trae este asunto

en otras ocasiones efectivamente hemos debatido este asunto pero nunca había sido upyd quien había planteado esta propuesta por lo tanto en primer lugar infórmense ustedes bien si aralar si izquierda unida trae este asunto como trajo en el pasado lo lógico y normal

a plantear sus propuestas y esto es lo que nosotros hemos hecho es decir nosotros hemos hablado de este asunto en este parlamento tantas veces como ustedes

es la primera vez que nosotros traemos este asunto y no sabemos si será la última seguramente no porque creemos en él

en estos cinco años se ha hablado de subvenciones al fútbol nosotros estamos en contra de las subvenciones al fútbol pero en todo caso representante

a este parlamento y lo discutimos se ha hablado de las subvenciones culturales nosotros estamos de acuerdo en que hay que subvencionar a la cultura

de la misma forma que le respondí al señor arana no estamos hablando aquí de los sindicatos pero si quiere

usted aquí la propuesta de suprimir las subvenciones a los sindicatos y lo hablaremos pero ahora no estamos hablando de eso estamos hablando de determinados privilegios

legales o determinado tratamiento fiscal del que disfruta la iglesia católica y este es un hecho

así lo ha reconocido que hay una serie de subvenciones a las

pensamos que un estado laico no tiene que subvencionar a ninguna confesión religiosa no se trata de tratarlas a todas por igual eso no es el laicismo

al margen porque las creencias religiosas dependen de cada uno

las creencias religiosas es un asunto privado y el estado tiene que mantenerse

es equivalente al estado totalitario me parece una barbaridad de dimensiones estratosféricas pero usted lo ha dicho aquí al revés un estado laico

democracia plena no es verdad que tienen privilegios las confesiones religiosas señor damborenea

al culto la residencia de los obispos de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas

sí están exentos nosotros proponemos que no estén exentos esto es lo que nosotros hemos planteado lo mismo que hemos planteado en el congreso de los diputados sí lea usted

de transacción el punto número dos necesidad de distinguir las actividades de índole social o asistencial para que tengan los mismos beneficios fiscales que los que disfrutan cualquier otra entidad sin fin o ánimo de lucro pero que las actividades dirigidas

etcétera estos se mantengan al margen y no tengan ningún tipo de beneficio eso es lo que nosotros hemos planteado siempre aquí y en el congreso de los diputados y cuando votamos en contra de aquella propuesta de izquierda unida era o porque esto lo planteaban mal y no hacían esta distinción y le dije lo mismo hace un año o bien porque se quedaban corta y le dije al señor arana que la propuesta que ustedes habían planteado hace un día que habían planteado esta misma propuesta en el congreso de los diputados era una chapuza

distinguir bien los inmuebles que se destinan al culto de otro tipo de inmuebles que se dedican a otras cosas y como los señores de izquierda unida

por eso votamos en contra pero estamos de acuerdo con lo que aquí se señala esto es lo que nosotros hemos defendido siempre aquí y en el congreso de los diputados siempre nosotros decíamos precisamente en aquel debate en el congreso de los diputados que resulta necesario distinguir entre aquellas actividades de la iglesia católica y las distintas confesiones religiosas

o el proselitismo de la fe o los dogmas religiosos de aquellas otras de índole social o asistencial pues de no hacerse así

en peor situación que otras asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro lo que tampoco parece razonable esto era lo que decíamos en el congreso de los diputados

absolutamente de acuerdo en fin nos parece una iniciativa absolutamente fundamental que defiende que el estado tiene que ser laico que el estado tiene que mantenerse

y no subvencionar ninguna y ya digo defendemos lo mismo aquí que en el congreso de los diputados lea bien la enmienda transaccional que hemos firmado y especialmente el punto dos porque ahí está la clave del asunto los inmuebles destinados al culto no los puede subvencionar el estado y esto lo entiende cualquier persona que entienda de democracia esto es el estado laico que el estado se mantiene neutral ante todas las creencias religiosas ante todas ellas por eso puede ser que algunos inmuebles que se destinan depende a qué pueden

las mismas ventajas que determinadas fundaciones pero lo que no puede ser es que los inmuebles que están destinados al culto no paguen lo que nosotros consideramos que en un estado laico deberían pagar este es el asunto fundamental de esta iniciativa

los señores parlamentarios se van por los cerros de úbeda bien para situar la cuestión estamos hablando

de todas porque nos hallamos en un contexto de crisis en el que los ayuntamientos que han visto además seriamente mermados sus recursos económicos y sus posibilidades de recaudación han puesto encima de la mesa en la calle

el debate de la exigencia tributaria para con la iglesia católica y con el resto de confesiones religiosas no nos estamos inventando absolutamente nada ese debate ya está y los ayuntamientos ya han iniciado su particular cruzada en los tribunales y estamos asistiendo a este debate de la financiación de las confesiones religiosas

cuando a nivel institucional se están promoviendo regulaciones para evitar excesos de déficit

de treinta de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público se solicita por ese real decreto a los ayuntamientos

y por tanto esa repercusión en la ciudadanía va a ser importante y esa repercusión en las instituciones va a ser muy importante

administraciones locales se les está instando a incrementar el ibi

qué hacemos aquí discutiendo y debatiendo de que

que se exige por el estado a las administraciones locales a las administraciones más cercanas a la ciudadanía

se prestan servicios públicos fundamentales desde las administraciones locales de eso estamos hablando en el día de hoy

pública de las confesiones religiosas y cómo se ponía en evidencia clarísimamente una desigualdad de trato

de las propias administraciones e instituciones públicas con relación a todas las confesiones religiosas el estado entrega a la iglesia católica

millónes de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas asignaciones tributarias vía

por la financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico por transferencias para asistencia sanitaria y de obra social

para el mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local y ante situaciones excepcionales no debemos preguntarnos de tomar medidas excepcionales la fiscalidad es el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y la manera más directa

la solidaridad la cohesión social y la prestación de servicios públicos hoy el estado colabora económicamente con la iglesia católica y también lo hace

suprimiendo el trato discriminatorio que habían padecido estas durante siglos pero hoy más que nunca

debe ser equitativa y equiparable al esfuerzo que se está exigiendo a las administraciones españolas a las administraciones locales y a la ciudadanía en general no solo porque se ha establecido una política de recorte del gasto público

sino porque también se ha establecido una política de incremento de la imposición fiscal a las propias administraciones públicas y a la ciudadanía

ni pueden ni deben de estar exentas o ser ajenas al tema

porque estamos también de acuerdo en que hay obra social que realizan las confesiones religiosas incluida la iglesia católica es por lo que tampoco nos duelen prendas a los socialistas decir que durante ocho años

ese al que tantos algunos denostan en esta tribuna vía gobierno de españa cáritas recibió veintiséis millónes y medio de euros

daba a cáritas cinco millónes de euros pongamos en su justo término lo que subvencionamos y lo que no subvencionamos y que algunos dejen de alucinar y tomen tierra y otros sepan qué son servicios públicos que deben darse a la ciudadanía y qué no son servicios públicos
y son servicios privados muchísimas gracias eskerrik asko corcuera andrea

confundido o que he puesto en paralelo el estado laico con el totalitario nada más lejos de mi intención yo lo que le he dicho es que el estado que tenemos ahora gobierne el pp o el psoe en la moncloa creo que es laico y que su propuesta era completamente totalitaria

no a la iglesia sino a ese cincuenta por ciento de vascos que

acuden a cualquier tipo de templo o centro para practicar su fe o sus creencias religiosas

si lo practican el cincuenta por ciento de la población es privado pero pasa a ser público o pasa a ser público o pasa a ser tan importante el volumen de gente que practica esa creencia religiosa que creo que se le tiene que tener en cuenta porque también usted sabe que si no hay subvención esa práctica sería imposible es decir que

como su ponencia que quiere la autofinanciación completa de las iglesias estamos diciendo de un plumazo que hay un cincuenta por ciento de la población que no va a poder

de euskadi que reconoce que como mínimo una vez al mes acude a algún tipo de centro

de toda influencia eclesiástica o religiosa el hecho de que

el que depende es el subvencionado nunca el subvencionador entonces se puede ser laico a la vez y subvencionar a la iglesia es perfectamente legal y perfectamente entendible

su tesis era que estamos en crisis y que había que adecuar más o menos la crisis también al tema de la iglesia

si dijeran como estamos en crisis que asuman el recorte que asuma el resto de la población o el resto de la administración pública

todo de repente y claro quitarlo todo de repente eso no es una cosa temporal es

a no tener ninguna y eso creo que no es por la crisis eso es por un tema ideológico entonces yo vuelvo atacando el tema ideológico a lo que he dicho antes definición de laicismo se puede ser laico y subvencionar a la iglesia a la vez no es ningún problema de verdad

muy bien nos ha recordado esto es para suprimir los privilegios de la iglesia católica es a lo que usted ha venido usted aquí hacer ese discurso contra la iglesia católica pues muy bien ya sabemos que la izquierda en este país sobre todo la muy española siempre ha tenido una obsesión

tiene que volver a ese sistema nos dice

por qué nos habla usted del ibi si usted en su propuesta no habla del ibi no cita el ibi en su enmienda de transacción no habla del ibi

no ustedes han venido a hablar de la financiación de la iglesia católica no del ibi y

usted con perdón no ha venido a defender que el estado tiene que ser laico primero

si tendríamos que depender de su defensa pues en estos momentos

en esa materia de ningún tipo y aparte de que no lo ha hecho especialmente bien porque usted confunde su ideología

yo no sé por qué ustedes vamos a ver

les da tanta vergüenza del señor rodríguez zapatero por qué ustedes nos dicen

que hay que reformar el acuerdo del tres de enero del setenta y nueve pero si ustedes ya lo reformaron

oiga y nosotros lo apoyamos nosotros votamos a favor también

por qué lo ocultan qué vergüenza les da lo hizo peor

cuál es el problema que tienen ustedes con lo que ustedes han hecho cuando están en el gobierno en esta materia es lo que rige hoy

rige el suyo el que ustedes negociaron con la santa sede

y señor maneiro rosa díez votó en contra voto en contra en el congreso de los diputados y el partido socialista votó en contra en el congreso de los diputados hace un año y ustedes nos vienen aquí

este discurso pues muy bien que la iglesia católica es muy mala y ustedes son muy buenos es lo que nos han venido a

nos parece muy bien o mal verdad

políticamente y nosotros creemos que la fórmula de colaboración que existe hoy que fue la que pactó el partido socialista obrero español es correcta adecuada encaja dentro de la constitución para todas las confesiones religiosas y por lo tanto
seguiremos apoyando el acuerdo al que llegamos con el partido socialista obrero español en esa materia muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

seguimos debatiendo sobre justicia parece que es de justicia debatir sobre la justicia como ustedes ya saben y así consta en nuestra proposición no de ley

diseñó un mapa judicial estructurado en partidos judiciales

y poblacionales y con el objetivo principal de acercar de manera importante la justicia a la ciudadanía y sobre todo

de la litigiosidad provocado fundamentalmente por la mayor conciencia

también por la desaparición de vínculos sociales y políticos restrictivos de la libertad individual y del derecho de defensa

por el control democrático de los defectos de funcionamiento de las instituciones públicas por la mayor conflictividad social derivada de la creciente complejidad democrática y de los episodios de crisis económica tal cual hoy

derecho según se recogía expresamente en su exposición de motivos cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley el gobierno

de españa venía barajando la posibilidad cierta de utilizar como

demarcación judicial que fue aprobado por el consejo general del poder judicial el tres de mayo de dos mil doce que planteaba fundamentalmente

drástica de los partidos judiciales concretamente a nivel del estado pasaba de los cuatrocientos treinta y uno a ciento noventa y nueve y en euskadi esto se concretaba con una reducción superior al cincuenta por ciento

a seis y eso es lo que realmente nos preocupa de lo que hemos venido a hablar concretamente desaparecerían tres en bizkaia getxo balmaseda gernika

y desaparecería uno en álava concretamente el de amurrio ha habido múltiples

pronunciamientos en orden a la posición de no

y eibar tiene añadido además que aparte de desaparecer los juzgados de primera instancias e instrucción que son los que en

tiene un juzgado de los social que funciona estupendamente bien

ese objetivo de acercar la administración de justicia como servicio público a la ciudadanía y esto unido a la liquidación de tasas para litigar no es otra cosa a nuestro juicio que un ataque frontal al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en beneficio

que lo de siempre más recortes más recortes con la excusa de que hay que modernizar y racionalizar la administración de justicia lo que realmente se produce y lo que realmente se pretende y además se produce y esto es lo peor de todo

conseguir un ahorro económico a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos se consigue también reducir las inversiones en la administración de justicia que es a nuestro juicio un servicio público esencial del estado del bienestar con el que se pretende acabar alejar

del ciudadano lo que supone más gastos más tiempo y por lo tanto muchas más trabas para acudir a la tutela judicial a los tribunales afecta también al tejido socioeconómico de esas poblaciones

e inversiones múltiples alrededor de los juzgados afecta también al

reducciones de plantillas y movilidad geográficas de trabajadores y trabajadoras

se deslocalizan los municipios más pequeños esta manía porque no se le puede denominar de otra manera de concentrar en las capitales todos los servicios pues lo que producen es que al final

para conseguir todos los servicios que necesito a cualquier

en fin son múltiples las consecuencias de una

sin un estudio previo de modo y manera que de entrada a lo que nosotros nos toca es manifestar nuestra absoluta oposición a este informe de modificación a este proyecto de modificación basado en este informe sin embargo hay que decir también señorías que parece y digo parece porque

que no va a ser ese informe al final del consejo general del poder judicial el paradigma para establecer criterios y una nueva ley de planta si no que en su caso se van a tener parece como digo repito en cuenta

que de entrada y a beneficio de inventario parecen menos radicales y traumáticas pero por si acaso por si acaso como digo

postura y lo que pretendemos defender con nuestra proposición y esto

en relación con este o con otros asuntos relacionada con la justicia esto defender la justicia como un servicio público lo que implica es primero el acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales por otra parte hay que señalar que no solamente porque lo diga yo sino porque lo dice la ley es necesario el consejo además lo dice la propia ley del consejo general del poder judicial en el artículo treinta y dos punto cinco es necesario

de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en esta materia y también el consenso con los ayuntamientos para conseguir una adecuada reordenación que lleve a una administración de justicia más eficiente el asunto es un asunto de principios señorías la reforma no puede ni debe centrarse en una simple

de partidos judiciales con el argumento de unificar instalaciones y

supondría y esto es algo obvio la pérdida de las garantías básicas judiciales para miles de ciudadanos

como servicio público esencial para la ciudadanía lo que toca y lo que tocaría en su caso es modificar por ejemplo ciertos procesos judiciales que están absolutamente obsoletos no les voy a recordar que hubo una modificación de la ley de enjuiciamiento civil en el año dos mil pero que venía de una ley que todavía sigue sigue por ejemplo en materia jurisdicción voluntaria siendo

vigente que es una ley del año ochenta y uno de mil ochocientos ochenta y uno no del ochenta y uno del siglo pasado sino de hace dos

pretendiendo modificar esperemos que con éxito la reforma de estas demarcaciones como decía

la panacea para es decir la demarcación no es el paradigma para modificar la administración de justicia y hacerla más eficaz y cercana a los ciudadanos

integral de modernización de la administración de justicia la reorganización del partido judicial como unidad básica de la actuación jurisdiccional está suscitando también como ustedes saben

abogados procuradores ellos entiendo debería ser escuchados la justicia de primera instancia

próximo a los ciudadanos y por tanto debe ser imprescindible compaginar la reordenación con el hecho de garantizar una justicia ágil eficaz y cercana todas estas cosas que hemos repetido siempre son en definitiva el fondo de la cuestión que nos ocupa y por eso entendemos que lo que hemos firmado

y el partido socialista no puede no tiene nada para lo cual

no puedan adherirse por eso yo pido sobre todo la adhesión del resto de los grupos a la enmienda transaccional que como digo lo que garantiza es que a la vista de que no existe un procedimiento distinto ni existen estudios

con este procedimiento única y exclusivamente de reducir partidos

de evitar gastos parece razonable solicitar el mantenimiento de todos los

razonablemente bien es muy complicado entender que solamente con el hecho de reducir partidos judiciales

parece absurdo pensarlo así hablamos también de los posibles

tribunales de instancia en fin este es un debate

señorías hay muchísima gente concernida gente que efectivamente no acude a la justicia a lo largo de su vida pero hay

que necesita una justicia rápida que necesita una justicia eficaz y eso alejando a la justicia de los ciudadanos que son

se va a conseguir por tanto solicito el apoyo de la cámara para esa enmienda transaccional que hemos firmado con el

en la que fundamentalmente lo que se viene a decir es que sin que se mantengan los partidos judiciales de la

manteniendo igualmente todos y cada uno de los juzgados que forman parte de esos partidos judiciales y en eso hago referencia específicamente al juzgado de lo social de eibar que

con criterios de concentración de los que luego hablaré en su caso y que para

modificar esta demarcación y planta a los juzgados de

los criterios como manda fundamentalmente la ley orgánica del poder judicial los criterios de las propias comunidades autónomas y de los ayuntamientos afectados repito señorías solicito el apoyo de toda la cámara para esta enmienda transaccional para esta proposición no de ley y por lo tanto

gracias señora presidenta buenos días a todos como expresa la proposición

diseñó un mapa judicial mapa que debe de ser modificado para adaptarse a la realidad y necesidades de los ciudadanos del siglo veintiuno pero que dicho mapa debía ser modificado y que dicha ley debía ser modificada no es una cuestión

puso de manifiesto dicha necesidad así con fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve el consejo de ministros del gobierno socialista constituyó una comisión interinstitucional presidida

en los trabajos de dicha comisión del propio gobierno socialista clara dicha comisión tiene como cometido determinar estudiar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva ley de planta y demarcación judicial

en el que como premisa se señala que desde la aprobación de la ley anterior

por ello señala que resulta inaplazable la reforma de la planta y demarcación ya que ni nuestra realidad social ni la actual configuración de la administración de justicia es la del momento en el que se aprobó la ley y que era necesario por tanto adaptar la organización judicial a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades

la primera de las cuales es la superación del partido judicial como base del modelo este responde a un contexto histórico de dificultades de comunicación y desplazamiento que no son las actuales por ello considera que lo adecuado en este momento

con la de evitar la dispersión territorial de medios personales y materiales

en contra de los principios de racionalidad economía y aprovechamiento de los recursos públicos

conveniencia de superar la división actual en partidos judiciales propia según el informe del siglo diecinueve entre sus recomendaciones también está la de extender la organización colegiada es decir de transformar los tradicionales juzgados en un único tribunal con el número de jueces que sean precisas y situar en los núcleos urbanos importantes no en las capitales

ajustándose de esta forma en lo relativo a la organización judicial a los países de nuestro entorno en orden a alcanzar unas mayores cuotas de eficacia este informe

al ejecutivo socialista por el ministro de justicia en abril de dos mil diez y por otra parte

es el propio partido socialista el que señala que la modificación de la ley de demarcación y planta es una tarea inaplazable ya que el modelo resulta caduca desfasado por lo que es necesario adaptarlo a las necesidades actuales como medida de optimización de recursos y estoy

la intervención del portavoz socialista en aquel debate estas manifestaciones están basadas en el informe que como le decía había sido elaborado por la comisión y por ello entre las propuestas de resolución presentadas por el grupo socialista está la de instar al consejo general del poder judicial a colaborar en los trabajos dirigido al diseño ese nuevo mapa de planta y demarcación

sobre el que ahora los socialistas se rasgan las vestiduras por lo tanto como les decía vemos que la introducción de este debate tiene un autor muy concreto

al partido socialista eso sí al partido socialista en el gobierno cuestión esta que conviene

dependiendo el papel que los ciudadanos le hayan otorgado introducido el debate de la necesidad de modificar la organización judicial y compartiendo el mismo el partido popular

una de las cuales iba dirigida a abordar el estudio y en su caso la propuesta de redacción de la ley orgánica del poder judicial y ley de demarcación y planta y el ministro de justicia en su comparecencia ante la comisión de justicia el día siete de mayo

pivota sobre esa idea previa sobre la necesidad de adaptar la organización judicial a los nuevos tiempos dado que desde la fecha de la ley anterior y como decía el informe del dos mil nueve la población ha aumentando un quince por ciento y la litigiosidad un

en dicha comisión expone las conclusiones de esa comisión de expertos y pone de manifiesto en su intervención dos conceptos claves la flexibilización y la concentración buscando una mejor asignación de recursos materiales y personales una mayor agilidad de respuesta y una mayor especialización

recogiendo este propuesta de la comisión de expertos propone superar el partido judicial

es decir conclusiones muy parecidas las de este segundo informe que la del informe surgido con el gobierno socialista

desde un primer momento no solo en esta comisión sino también a preguntas en plenos de control el ministro de justicia aclaró que este nuevo modelo no implicaba en absoluto la desaparición de los órganos judiciales

de los mismos con criterios de especialización y ayer mismo en el congreso de los diputados volvió a remarcar esta cuestión resulta curiosa la iniciativa

socialista como se lo ha dicho antes también al señor damborenea que no sé si va a pedir la palabra por alusiones dado que aquí

todo lo sucedido con anterioridad o no se recuerda o se expone vamos a decirlo de forma suave de forma distorsionada

no existe en la mente socialista pero ya les digo pueden tener amnesia pero eso no significa que también la tenga la hemeroteca o el diario de sesiones del congreso

hace usted referencia en la iniciativa y al que ha hecho referencia aquí ese informe del consejo general del poder judicial se elabora como consecuencia

en el congreso y dicho informe por cierto no fue aprobado en el pleno del consejo general del poder judicial sino que fue aprobado por cuatro representantes de los cuales tres habían sido nombrados a instancias del partido socialista

el representante del grupo socialista señala que ese informe del consejo general del poder judicial se había emitido por su cuenta y riesgo ya les digo

de estudio porque leyendo al diputado socialista uno pensaría

y no menciona lo que yo digo que ese informe es elaborado a instancias de una propuesta del grupo socialista

de manifiesto que con todos los respetos a ese informe del consejo del poder judicial no le gustaba el sistema propuesto por dicho informe que suponía como usted ha dicho la reducción de los partidos judiciales de cuatrocientos treinta y uno a ciento noventa y nueve pero que seguía manteniendo dicho informe a pesar de la reducción el sistema de partidos judiciales

una mayor conformidad con la propuesta realizada en esa comisión que como le decía coincidía con la de la anterior dirigida a que la demarcación sea provincial

sedes judiciales en españa como le decía ayer mismo en la sesión de control volvió a insistir en que no se va a cerrar ninguna sede judicial

y complementarlos con un criterio de especialización a partir de la creación de los tribunales de instancia el proyecto todavía no existe lo que existen son informes algunos con los que el gobierno está más de acuerdo y otros con los que está

no es la opinión del gobierno eso no es el texto del gobierno el texto del gobierno será el que se apruebe en el consejo de ministros y que después sea remitido a la cámara eso sí acompañado de los informes preceptivos que como usted decía

de remitirlo como se ha hecho a múltiples instituciones no existe proyecto pero ya hay una iniciativa para oponerse al proyecto

además de esa amnesia selectiva ustedes últimamente tienen otra característica señores socialistas y es esa política preventiva a la que últimamente tan acostumbrados nos tienen

se hubiera aplicado antes cuando gobernaban pero cuando gobernaban

ahora eso sí cuando ahora están en la oposición ya no es que ejercen oposición contra el gobierno

cuando estaban en el gobierno llevan la oposición al extremo de que ahora que

son otros se oponen no solo a los proyectos aunque sean muy similares

su postura ya no es la oposición responsable su postura es la oposición por la oposición porque se oponen frente a todo frente a una idea frente a un anuncio frente a lo que sale en un periódico frente a lo que han oído en una radio

como les decía se oponen incluso ante ustedes mismos porque tienen

o han perdido el retrovisor o es que tienen el cristal de atrás totalmente empañado por eso lo que les aconsejo es que conecten la luna térmica para que ese cristal se les desempañe recuperen el retrovisor

dejen de hacer esa política preventiva y esa oposición preventiva y aunque les cueste se pongan hacer una política y una oposición responsable nada más eskerrik asko llanos andrea

apuesta y trabaja por una justicia al servicio de la ciudadanía uno de los retos fundamentales del actual administración de justicia una mayor cercanía a la ciudadanía y conseguir impartir una justicia cada vez más ágil eficaz y transparente y en aras a la consecución de ese objetivo

la descentralización de la justicia con una iniciativa concreta instar la modificación de la ley orgánica del poder judicial para que sea el gobierno vasco el que diseñe la planta judicial y las programaciones anuales y determine la creación de juzgados en euskadi

una nueva demarcación judicial no ayuda para nada en la consecución de una administración de justicia cercana a la ciudadanía porque en lugar de facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia se les van a poner trabas el actual gobierno con su obsesión

no es extraño que vea positiva la concentración de partidos judiciales pero no debemos olvidar que ya en la anterior legislatura el veinticuatro de abril del dos mil nueve

una comisión institucional con el cometido de determinar estudiar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva ley de planta y demarcación judicial la comisión como ha mencionado también la señora llanos presentó su informe

cinco recomendaciones como consideración previa quiero destacar que

requiere debate público y acuerdo y se debe abrir por tanto un proceso de formación de consensos para la materialización de las cincos recomendaciones voy a leer únicamente la primera de las

superación del partido judicial como base del modelo el acceso a la justicia precisa de proximidad pero precisa que las actuales infraestructuras permitan obtener resultados análogos a los del pasado con una menor dispersión territorial

necesariamente a la concentración hay que explorar formulas que superen la división actual en partido judiciales e implantar estructuras territoriales más

el informe elaborado por el consejo general del poder judicial en mayo del dos mil doce como se ha dicho toma como base precisamente ese informe en el que se prevé la

y en concreto y en lo que a nosotros se refiere ya ha hecho la señora gallastegui el repaso de cómo quedaría nuestro mapa por lo tanto

ella ha comentado el grupo nacionalista vasco tanto en esta legislatura como en la legislatura precedente

contrario a la concentración prevista y la consiguiente desaparición de partidos judiciales y puedo decir con orgullo un representante del partido nacionalista vasco el que logró arrancar un acuerdo un compromiso al gobierno socialista en el sentido de mantener la demarcación tal y como está actualmente configurada y no será tampoco el partido nacionalista vasco el que se

judicial sobre todo cuando dicha petición provenga de los jueces y magistrados pero

y cito textualmente cualquier modificación de la demarcación judicial debe ser realizada entre el gobierno

los consejos de gobierno las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos previo un análisis en profundidad del consejo general del poder judicial

la actual configuración de la demarcación judicial existente ha asegurado y asegura el equilibrio

de los ciudadanos con los órganos judiciales y la necesidad de evitar una excesiva dispersión de recursos humanos y medios materiales no obstante insisto en que no nos negaremos a debatir y concertar

por los estudios oportunos y acordada en los conciertos necesarios entre los actores a los que he hecho referencia

órganos judiciales lo que ciertamente carece de sentido si queremos actuar bajo los parámetros de eficacia y eficiencia y del máximo rigor en la gestión de los recursos públicos es que la administración vasca tenga una mera función

a lo que el tribunal constitucional ha denominado administración de la administración de justicia de tal forma que su función simplemente sea la de dotar de recursos y medios al ejercicio de la función jurisdiccional que sea quien dote de infraestructuras

que sea quien ponga en marcha las nuevas aplicaciones

etcétera y en cambio no pueda decidir autónomamente

y planta dentro de su propio territorio la atomización de la competencia judicial entre diversos actores impide que la misma pueda ser realmente

la hacemos no solo como partido nacionalista sino para realizar una mejor gestión de los recursos públicos es la misma fundamentación

no solo por razones políticas y jurídicas también por razones sociales humanitarias y de buen gobierno porque tal y como ha manifestado el señor erkoreka aquí presente a veces ocurre que pese al dinero y al esfuerzo invertido por el gobierno vasco en desarrollar el itinerario de inserción socio laboral

la dirección general de instituciones penitenciarias decide trasladarle a una prisión radicada en andalucía con lo que todo el trabajo llevado a cabo y todos los recursos

en lo referente a la constitución de los consejos autonómicos del poder judicial solicitamos que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto de autonomía

a que sea el gobierno vasco quien diseñe la planta judicial y las programaciones anuales y determine la creación en euskadi la constitución de los consejos autonómicos del poder judicial no es una reivindicación nacionalista es una cuestión de mejora organizativa es necesario que el poder judicial

otros poderes del estado se acomoden a la estructura de un estado compuesto la constitución de los consejos autonómicos no solo la pedimos nosotros lo dicen además dos libros blancos para la reforma de la justicia y del consejo general del poder judicial

que instamos al gobierno de españa a que impulse las medidas legislativas necesarias para hacer posible la constitución de los consejos autonómicos besterik ez

gracias presidenta nosotros no creemos que una posible reducción

tenga que significar necesariamente tal como algún grupo ha planteado recortar nada creo que el objetivo de cualquier reforma debería ser y podría ser garantizar un mejor servicio de justicia ese

el objetivo fundamental la nueva oficina judicial apoyada por el partido socialista solo puede implantarse en juzgados de un cierto tamaño por lo que nos parece contradictorio defender a la vez el mantenimiento de los partidos judiciales tal cual

debería poder plantearse y nos parece razonable que este asunto se debata

sin excesivos frentismos digamos creo que este es un asunto que podría plantearse

plantear la reducción de los partidos judiciales tenga que significar necesariamente recortar nada creo que lo planteado por algunos grupos

de la justicia según la cual cada pueblo tenía que tener su alcalde su cura y también su juez lo importante es la profesionalidad de los jueces y la calidad y la eficacia y la rapidez de la justicia y no tanto digamos su proximidad

pues hoy en fin la mejora de las redes de carreteras medios de transporte hace que sea mucho más fácil desplazarse sin que tenga que tener sentido mantener estructuras en muchos casos heredadas del siglo diecinueve yo

en el apartado relativo a esta propuesta lo siguiente la propuesta tiene una vocación marcadamente provisional

sobre una cuestión cuya importancia exige un sosegado análisis y la participación de todos los interesados con el fin de lograr el resultado que mejor satisfaga los intereses del justiciable y que podrían coincidir o no

bastante razonable que se inicie un proceso de debate sobre una cuestión

efectivamente sosiego análisis sosegado y la participación

ninguna enmienda teníamos intención de haber presentado una enmienda que aproximadamente podría haber dicho lo siguiente nosotros

propondríamos que en el proceso de debate en curso sobre el diseño de los partidos judiciales la reestructuración de los mismos atendiendo a las exigencias de la nueva oficina judicial la racionalización del trabajo y la especialización como presupuesto

y centralización de los partidos judiciales pueda suponer un obstáculo al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos digamos que en esta enmienda que nosotros finalmente no hemos planteado se recoge lo que upyd piensa sobre esta materia por esta nosotros no votaremos a favor de esta enmienda que han firmado el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos no votaremos a favor de esta enmienda

gracias de nuevo presidenta buenos días de nuevo señorías bueno vamos a ver yo

a provocar estas

porque la intención fundamental de la proposición no de ley es simplemente manifestar la apuesta del parlamento por una justicia

por una justicia que en fin permita que todas aquellas personas que tienen necesidad de conseguir la tutela judicial lo tengan a mano no lo tengan cada vez más lejos sino cada vez más cerca hablaban

representantes de los grupos políticos acerca de la prevención bueno la prevención yo

no recuerdo ahora el nombre de este señor que fue muy famoso en su época y que creo que todavía sigue teniendo un programa pero aquello de prevenir más vale prevenir que curar siempre ha sido una buena máxima

para evitar situaciones que desemboquen en algunas situaciones que no tengan solución alguna y esto es lo que pasa muchas veces con el

las cosas y los consensos necesarios por eso lo único que se pide desde esta proposición no de ley es

unos estudios suficientes que determinen con claridad meridiana que

vaya a ser mejor para los justiciables

y no creo que esto sea una cuestión menor fundamentalmente porque hace un año aproximadamente con el concurso también del partido popular y a la vista

se presentó y se apoyó una declaración institucional en el ayuntamiento de llodio o en el de amurrio no estoy muy segura para solicitar del gobierno que desapareciera el partido judicial número uno de amurrio por tanto

yo no tengo porque recordarle al partido popular

porque entre otras cosas se dedica a recordarnos las todos los días pero en cualquier caso señorías yo no sé si se han leído ustedes bien la enmienda me refiero a los grupos que no la han apoyado porque la enmienda lo que dice

que el parlamento vasco se muestra favorable a la justicia de proximidad es decir que se preocupa por la justicia de nuestros ciudadanos y que en instar al gobierno de españa al mantenimiento de los partidos existentes conservando los juzgados

también le insta a que cualquier modificación que se haga en el futuro se haga con criterios de racionalidad y que la modificación de esas demarcaciones que se pretenda

concernidas es decir con nuestros ayuntamientos y con nuestra comunidad autónoma no veo por ningún sitio cuál es la razón para no poder apoyar esta enmienda transaccional que finalmente lo que viene a decir es que el gobierno encargado de hacer la modificación

popular busque el consenso necesario para que esa

sea la mejor y la que más garantice de alguna manera el fácil acceso y la comunicación de los ciudadanos con la administración de justicia ni más ni menos

no veo señora llanos ya sabe usted que yo le tengo un afecto que hay veces que pienso que por qué porque

como se pone usted para decirme esas cosas fundamentalmente cuando podemos estar de acuerdo

porque lo cierto es que cualquier modificación legal que se plantee desde cualquier partido que esté en el gobierno que se razonable con los criterios y que sea compatible con los criterios de mejorar

todos los servicios públicos tendrá al partido socialista

no somos nosotros los que los proponemos que será lo normal pero en cualquier caso

se lo piensen en relación con

el último punto de la enmienda transaccional estamos hablando de terminar el desarrollo autonómico

en materia legislativa y ejecutiva no veo por qué no toca sobre todo cuando estamos hablando de consejos

me voy porque se me acaba el tiempo y solicito de nuevo

gracias de nuevo señora presidenta señora gallastegui

evidentemente usted presenta unas cosas con las que este grupo no tiene más que discrepar y usted

que ha puesto de manifiesto con la necesidad de mejorar la administración de justicia totalmente de acuerdo con que es necesario una mayor proximidad lo que no sé es a qué proximidad se refiere usted cree que los juzgados

tienen ámbito provincial y usted cree que no están próximos a los ciudadanos en esa proximidad que yo creo que dice geográfica

hombre yo creo que los ciudadanos no están todo el día en los tribunales probablemente puedan tener más opción de queja los profesionales que esos sí están todos los días

que permita una mejora de la calidad de la justicia que con una justicia más próxima geográficamente y

podemos estar de acuerdo si también lo ha dicho la representante del partido nacionalista vasco y que es necesario contar con todos si ese borrador que ha salido de la comisión se ha mandado a la fem

se ha mandando a los tribunales de justicia se ha mandado al consejo de la abogacía a la representación de los procuradores al resto de operadores jurídicos van a tener los informes preceptivos se va a consultar con las comunidades autónomas claro que se va a consultar es más es una ley

del suficiente calado y de la suficiente importancia porque es una de esas leyes que lo suyo es que se mantengan en el tiempo

entra o sale sino que se mantenga en el tiempo porque ello será una garantía también de la seguridad jurídica que por eso el señor gallardón lo que ha señalado es que se pretende que se acabe antes de finalizar esta legislatura por ello se está llevando a cabo un procedimiento de consultas que no se están llevando con otras leyes

y usted habla de consensos hombre lo que pasa es que llegar a un consenso con el grupo socialista no me negará que es complicado porque es complicadísimo porque cuando uno está partiendo de las mismas premisas de las que partía el gobierno anterior que le vuelvo a decir de esa comisión constituida en el dos mil nueve estaba presidida porque la actual esa comisión de expertos actual sus trabajos están coordinados por el secretario de justicia

pero la anterior estaba presidida por el secretario de estado de justicia luego la implicación

y llega a una serie de conclusiones sobre las que pivota también el informe de la comisión de expertos y sobre las que el señor gallardón ha dicho que está de acuerdo pero claro cómo vamos a consensuar con ustedes si ustedes ahora están en contra de lo que ustedes aprobaron cuando estaban en el gobierno es muy difícil llegar a un consenso es que vuestra enmienda parte del mantenimiento

que la comisión anterior en su informe y la comisión de expertos actual está diciendo que es el sistema que hay que superar

lo cual no quiere decir que vayan a desaparecer órganos judiciales

las salas de gobierno de cada tribunal las que decidirá cuántos y en función de la especialización cuántos van a estar

ese va a ser el sistema el sistema es un sistema distinto porque todos estamos de acuerdo en que

tiene que ser mejorada que desde luego tiene que ser un servicio de calidad pero todos estaremos también de acuerdo en una optimización de recursos lo que ocurre es que esa optimización de recursos que ya le digo ustedes el grupo socialista en el dos mil diez hacía referencia que era necesario cuando esa optimización de recursos lo dicen ustedes es que son muy bueno gobernantes

estamos a favor del recorte y es un recorte sin más

y entonces claro llegar a un consenso con ustedes es harto complicado y con relación a los consejos autonómicos yo no sé si son una reivindicación nacionalista o no

el diario de sesiones del congreso junto con la audiencia nacional que también salió quiénes lo mencionaban amaiur

eso son los que mencionaban los consejos autonómicos y los consejos autonómicos

cuando se esté debatiendo la ley y no vamos a apoyar esta iniciativa porque esta iniciativa está ya presuponiendo una serie de cuestiones que si

a un consenso a hablar entre todos y a decidir entre todos pues hombre si ya estamos estableciendo una serie de premisas previas y condicionando ese diálogo

que esa sea la forma más correcta nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

para nosotros los consejos de justicia deben ser órganos de descentralización del poder judicial

y a pesar de que la sentencia del tribunal constitucional sobre el estatuto de autonomía de cataluña

esta podría habilitarse perfectamente en la reforma de la ley orgánica del poder judicial

ppko ordezkariari eskatu zion gauza bera eta hau da flexibilidad intelectual para que se materialice la constitución de los consejos autonómicos del poder judicial eta esan duzun moduan ordezkaria zen montserrat andreak esan zuen debate hori eman beharko dela en la reforma de la ley orgánica

y yo le vengo a solicitar señora llanos a que haga valer sus influencias para que esta reivindicación histórica sea tenida en cuenta y se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto de gernika eskerrik asko besterik ez eskerrik asko